gatazkatsuak en los últimos dos siglos han existido cuatro conflictos armados de distintas dimensiones características y efectos todos han tenido en su raíz la preservación o la recuperación de los derechos y soberanía del pueblo vasco para precisamente ser pueblo vasco ni más

al contexto en el que se ha desarrollado quiero traer unas palabras recientes de joseba y cito la transición que siguió al franquismo a finales de los setenta

de las expectativas de la sociedad vasca que quería más democracia aunque sí estaba acorde con la sociología franquista que era dominante todavía en muchas zonas de españa entonces hubo un sector político que se acomodó a lo que había y otro

con el franquismo y la resistencia el conflicto que con un poco de sentido común hubiera podido resolverse en dos o tres años se ha prolongado durante treinta años así hemos vivido un conflicto de corte político no convencional asimétrico con actores métodos y prácticas diversas un conflicto que

en la imposibilidad de todos los proyectos de llevarse a la práctica un contencioso que hunde sus raíces en una situación de evidente déficit democrático

en la absoluta negativa a que este país pueda decidir su organización política jurídica administrativa teniendo como

la voluntad libremente emitida de sus ciudadanos y ciudadanas un pueblo disgregado por leyes de partición y división administrativa

que rebajan apenas a la nada las aspiraciones de su ciudadanía un pueblo encorsetado por regulaciones diseñadas para negarle toda capacidad de regirse por sí mismo gaur egungo euskal herritarrok

antolatutakoak en segundo lugar y por contraste debemos expresar la situación

de las víctimas del estado el estado ha hecho empleo de la violencia ilegítima ya sea incitando y participando en tramas terroristas

por medio de sus aparatos y fuerzas y cuerpos de seguridad violencia que curiosamente no hay duda en calificar en esta misma casa en este parlamento como

director de derechos humanos del gobierno vasco quiso acercarse a este espacio desconocido olvidado de las víctimas del estado indicando que el reconocimiento de las violaciones de la injusticia de los hechos

no han sido tenidos en cuenta no se han desarrollado políticas públicas que tengan en cuenta su situación y en muchos casos los hechos ni siquiera fueron investigados con las suficientes garantías legales o judiciales tenemos donde trabajar pues

de violencia hay un autor un trasgresor los estados se han esforzado por perseguir y castigar

empuñando todas las armas que ofrecía la todopoderosa lucha antiterrorista las legales y las ilegales las legítimas y las ilegítimas

no como ciudadano sino como enemigo así se ha desprendido de garantías y derechos que le resultaban engorrosos ha dejado de lado

poniendo el énfasis en la adjudicación del castigo siempre el más severo siempre rayano en la venganza

eta gizagabekoak por otro lado en una cuarta categoría deberíamos analizar el tratamiento transgresores vinculados a la estrategia del estado quienes se ocuparon de ejercer la guerra sucia

de derechos humanos que han sido premiados con un perfecto engranaje de impunidad en conjunto el gal y otras expresiones de terrorismo de estado han causado sesenta y seis víctimas mortales y sesenta y tres heridos

han llegado a los tribunales qué decir de las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias perpetradas por cuerpos y fuerzas de seguridad del estado incluida

cuántos casos han investigado cuántos se han esclarecido cuántos perpetradores han cumplido condena por esos hechos contrarios a la legislación internacional de derechos humanos y contrarios al código penal hechos delictivos qué decir de la tortura

el trágico saldo de doce vidas en este pequeño país

década de los ochenta y principios de los noventa se dilucidaron algunos casos se condenó a un total de sesenta y dos guardias civiles y policías nacionales sesenta y dos torturadores convictos la mitad fueron inmediatamente indultados

nunca cumplió sus exiguas penas se puede negar la existencia de una práctica sistemática con semejante cobertura estructural

de apoyo e incluso de promoción de ascenso y de condecoración hacia los infractores del estado qué tipo de reconocimiento y reparación se da a sus víctimas dónde irán a buscar justicia sus familiares

para el desánimo en el ámbito donde más se ha avanzado sin duda

porque precisamente desde la sociedad se ha construido un carril de aceleración que demanda pasos determinantes y decisivos es de ahí

que pretendía asentar una situación de no violencia con garantías y un primer estadio de normalización política

paradigma de esa voluntad social compartida de cerrar un ciclo de confrontación

y sustituirla por dinámicas de diálogo y resolución de conflictos

a día de hoy la única hoja de ruta que indica el camino a proseguir más aún cuando la propia organización eta aceptó dar el primer paso de los planteados en dicha conferencia desde entonces los compromisos por ella adoptados se mantienen la comisión internacional de verificación ha comprobado que dos años tras la declaración de eta de un alto al fuego permanente general y verificable

definitivo a la violencia eta continua cumpliendo con sus compromisos

realizó una adecuación a ese nuevo estadio con un acto en el kursaal en el que invocaba

allí instó a reconocer el dolor y el sufrimiento de las diversas manifestaciones de violencia que se han producido en euskal herria la generada

como por las policías represivas y de guerra sucia de los estados español y francés zalantzarik gabe konponbidearen prozesuak gorabeherak ditu

es ahora y sobre estas bases donde se debe iniciar un debate sobre el modo

de manera ordenada desde un punto de vista técnico las aún vivas consecuencias del conflicto un proceso que debe ser soportado en el diálogo y en la negociación política por eso consideramos prioritario

y soberbias los gobiernos español y francés inicien contactos con la organización eta que conduzcan al desarme y a la disolución

como enfrentar la reintegración de presos y refugiados por último se tiene que dar solución a la cuestión de las víctimas en términos de igualdad

rehabilitación y sentando las garantías de que lo sucedido nunca más se repetirá oparoa bada ere ibilbidea esan daiteke

entendíamos que en una ponencia para sentar la paz y la convivencia

imponer ni condiciones ni textos precocinados a fuego rápido

y para exponer para enseñar y para aprender había que dejar tiempo a la empatía a la confianza a la apertura

con las cartas marcadas asegurándose así el resultado nosotros entendíamos que el trabajo a realizar

dos premisas fundamentales ninguna violencia ninguna imposición ni violencias ni imposiciones de ninguna clase

por absolutamente nadie consideramos

para desactivar absolutamente todas las expresiones de violencia también las que hoy en día prevalecen consideramos prioritario establecer la fotografía completa de vulneraciones cometidas

consideramos prioritario diseñar un plan de acción para desactivar la política penitenciaria las medidas de excepción la militarización del territorio medio del repliegue del ejército español y las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado la desaparición de imposición entendemos además que afecta directamente a la convivencia ya que esta es la que impide precisamente una relación respetuosa

y en la dignidad de las personas hoy

las aspiraciones proyectos anhelos de la ciudadanía

obstáculos y amenazas de incluso intervención armada como nos recuerda

que desde nuestro punto de vista imposibilita que se reconstruyan los puentes entre las diferentes sensibilidades ciudadanas a la fuerza

es la que pone en jaque la convivencia libre y pacífica de la ciudadanía vasca

y de la imposición que nos impide avanzar caerá para ello tiraremos fuerte desde las instituciones mientras se tira fuerte desde la sociedad

zabalik uztea litzatekeelako por supuesto no queremos negar luz a las violencias y vulneraciones de derechos humanos acontecidas

permitirían ni quienes lo han sufrido ni las generaciones venideras que tienen derecho

toda la verdad una lectura del pasado sin exclusiones sin olvidos cierto nosotros tampoco queremos mezclar equiparar

o atenuar la gravedad intrínseca de cada violación con otra de signo contrario simplemente queremos que estén todas reflejadas que la fotografía sea de conjunto en píe de igualdad y no oculta tras parcializaciones derivadas de autores acotaciones periodos categorías categorías que generalmente

a reflejar unas víctimas de primera categoría y unas víctimas de segunda categoría porque esa fotografía se da tan suficientemente ilustrativa

los hechos hablarán por sí solos hechos que nos remiten a las graves vulneraciones llevadas a cabo por una organización extra estatal

que además se comprometió ante la comunidad internacional a respetar

proteger promover los derechos humanos y que mientras firmaba esos pactos y tratados se lanzaba su vulneración una vulneración trataría de minimizar de esconder de hacer desaparecer para generar la ficción de que jamás existió una actitud impostada una falacia que cae por su propio peso ante un análisis diáfano de la realidad la realidad la terca realidad esa

eh bildu considera preciso volver a erigir los puentes debemos asegurar que lo que ha acontecido nunca más pueda repetirse debemos establecer las garantías de ellos se habla de reconciliación reencuentro reintegración

resultan demasiado lejanas en este país si es que alguna vez

en su búsqueda y afianzarlas sobre nuevas bases un futuro sin imposiciones en el que la voluntad ciudadana libremente expresada sea la única garantía de cualquier proyecto

es por lo que eh bildu muestra su total disposición para trabajar etorkizunhurbil batean dugun erronka izango da

buenos días a todas y a todos buenos días señores consejeros señor lehendakari debo

la justificación expresada por eh bildu en la justificación de su iniciativa para plantear este pleno monográfico es

eh bildu pretende repartir culpas mezclar lo que ellos llaman diferentes expresiones de violencia defender la teoría del conflicto político que legitima y finalmente justificar la violencia terrorista de eta que es lo que básicamente ha vuelto a hacer hoy aquí eh bildu justificar la violencia terrorista de eta esto es lo que básicamente hace eh bildu en la justificación de su iniciativa y lo que ha hecho en su discurso de hoy pretender justificar

viene a decir algo así como lo siguiente eta fue solo una de

ha vivido euskadi y es culpa de todos que se produjera porque en lugar de enfrentarnos a ella como muchos ciudadanos hicimos teníamos que haberles dado la razón de ese modo habríamos evitado sus asesinatos sin embargo

eh bildu miente y miente para blanquear su historia porque sabe que ellos son corresponsables de la violencia que eta desplegó contra una parte

hoy en euskadi es indispensable decir y contar la verdad para que no tengan éxito quienes pretenden confundir y engañar hoy en euskadi es indispensable decir y contar la verdad de lo ocurrido en euskadi y en el resto de españa durante las últimas décadas y en concreto

esto es la pretensión de la banda terrorista eta de imponer su proyecto político totalitario al conjunto de la sociedad utilizando para ello el asesinato la extorsión y el secuestro hoy en euskadi es fundamental contar la verdad y utilizar el verbo apropiado

por un lado que se olviden cuanto antes las fechorías de eta y lograr de este modo impunidad para los criminales y por otro lado que su historia inventada sea aceptada como cierta o real por tanto parto de un propósito básico fielmente lo ocurrido para a partir de ahí construir el mejor futuro posible sin eta sin impunidad y sin cambalaches antidemocráticos durante décadas hemos sufrido el terrorismo perfectamente discriminado de eta un terrorismo que ha provocado

miles de heridos y chantajeados e incontables ciudadanos expulsados del lugar donde querían vivir en ese repugnante quehacer diario herri batasuna batasuna y el resto de marcas de la izquierda abertzale han sido las acompañantes leales y fieles

los voceros de los delincuentes los servicios auxiliares de la banda los que justificaron y nos explicaron entre comillas cada uno de los asesinatos

los cómplices voluntarios de la estrategia etarra para alcanzar el poder y excluir a los no nacionalistas ha sido y es una organización mafiosa extraordinariamente cruel ha asesinado a militares a guardias civiles a policías nacionales

ha asesinado a hombres mujeres y niños ha asesinado

trabajadores jubilados personas en paro periodistas catedráticos y representantes políticos eta ha asesinado y ha atacado a todos aquellos que se interpusieron entre la banda terrorista y sus objetivos eta asesinó

un chaval de menos de treinta años tras tenerlo dos días secuestrado de pies y manos eta asesinó el treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho a alberto jiménez de cerril de treinta y siete años y a su esposa

de treinta y nueve años dejando huérfanos a tres niños de cuatro siete y ocho años centenares de historias como estas podíamos contar y todas ellas fueron justificadas por los servicios auxiliares de eta durante años

perfeccionamos los instrumentos del estado de derecho con el objetivo de derrotar a quienes pretendían imponernos un proyecto político a sangre y fuego se perfeccionó

la colaboración con francia se perfeccionó la legalidad vigente y la política penitenciaria y parte de la sociedad quitándose el miedo fue saliendo a la calle

sino a defender sus derechos políticos y sus derechos ciudadanos cuando se optó por defender sin complejos el estado de derecho fuimos bien

fuimos mal cuando se aprobó la ley de partidos y la ilegalización de todas aquellas formaciones políticas que no tenían otro objetivo más que acompañar a la banda fuimos bien cuando se les legalizó fuimos mal medidas como el respeto escrupuloso al estado de derecho

defendido por algunos por muchos representantes políticos y por diversos intelectuales y por centenares de ciudadanos que decidieron mantener la dignidad varios escalones por encima del miedo hicieron posible que lográramos ensanchar

en el país vasco el veinte de octubre de dos mil once eta anunció

según escribieron a través de un comunicado amenazante en todo caso

y continuó el proceso político judicial claramente precipitado y equivocado

en legalizar a su brazo político a día de hoy y no nos cansaremos de repetirlo eta sigue viva y amenazante emite comunicados no se ha disuelto no ha entregado las armas no ha pedido perdón público por sus crímenes

y no colabora con la justicia para resolver los trescientos veintiséis crímenes pendientes de esclarecimiento realmente y esto es algo obvio la banda pretende seguir condicionando las decisiones de los partidos políticos y el futuro de todos nosotros amaiur bildu eh bildu

se hicieron legales aunque en absoluto democráticos y obtuvieron buenos resultados en diferentes elecciones a día de hoy

incumplen claramente la ley de partidos la doctrina constitucional

siguen sin condenar la historia criminal de eta y siguen sin exigir su disolución definitiva e incondicional no hace mucho la portavoz de eh bildu

criticó la detención de delincuentes miembros de la banda terrorista con la argumentación de la actuación policial y judicial contra ellos es un obstáculo

continúan defendiendo los intereses de la banda hacen política en los parlamentos aquí los tenemos y defienden la impunidad de los criminales

y es un grave error de los demócratas no es demócrata quien sigue justificando las acciones criminales de eta dialogar y pactar con ellos como si fueran como nosotros como si fueran demócratas

se produzca donde se produzca en este parlamento en la diputación foral de gipuzkoa o en el ayuntamiento de vitoria es un grave error y al hacerlo

ética y democrática en euskadi obviamente hay muchas divergencias políticas uno puede ser nacionalista independentista autonomista o centralista uno puede ser de derechas o de izquierdas

o menos en eso consiste la democracia en defender

las ideas en las que uno cree las divergencias políticas se van o no resolviendo en función de las mayorías y de las minorías parlamentarias en función del debate político y de las propuestas que cada cual pueda defender

democráticas y sean defendidas de manera democrática otra cosa bien distinta es el terrorismo de eta ejercido contra la sociedad que no tiene otro objetivo más que imponer su proyecto político totalitario y acabar con la democracia

como normal es que haya quien continúe justificando las acciones criminales de eta como se sigue haciendo también durante el día de hoy en este parlamento y a día de hoy efectivamente eh bildu sigue justificando las acciones criminales de eta no exige a la banda su disolución definitiva

que los presos de eta encarcelados no deberían seguir presos es decir son inocentes es decir o no cometieron delitos o sus crímenes estuvieron bien en españa no hay presos políticos y quien diga que los presos de eta son presos políticos está justificando a eta

y los presos de eta no están en las cárceles por defender unas ideas

amenazar asesinar o pertenecer a banda terrorista es decir están en las cárceles por delitos perfectamente tipificados en el código penal insisto por lo tanto en españa no hay presos políticos

está justificando a eta creo tal como escribía hace unos meses pedro larrea que eta ha perdido la batalla operativa pero la lucha continúa escribía queda la más crucial de las peleas es el combate

el enfrentamiento entre los diversos relatos que ya hoy circulan en el seno de la sociedad vasca nos toca recordar escribía pedro larrea

de un conflicto secular y resuelto tal como pretenden hacernos creer y vender

sino el resultado de un proyecto político totalitario y nos toca recordar la verdad de los hechos y trabajar a fondo y lo más

y su proyecto político antidemocrático hacer justicia impedir que sea posible ningún tipo de impunidad evitar todo cambalache antidemocrático

de la sociedad hoy unión progreso y democracia vuelve a pedir un pacto político democrático para que los demócratas unidos nos neguemos a dialogar o a acordar con eh bildu mientras no condene a eta y mientras no exija su disolución definitiva e incondicional no podemos permitir un atisbo

ni aceptar la falsa idea del conflicto político como elemento justificador de las fechorías cometidas por eta no podemos tragarnos la mentira

que ejercieron violencia ilegitima de modo semejante y que provocaron víctimas iguales o parecidas en el bando contrario tal como eh bildu pretende tal como recientemente escribía josu ugarte

debemos enfrentarnos al riesgo de pasar página del negacionismo o de la banalización de los efectos no visibles de la violencia terrorista que perviven

en palabras de kepa aulestia las instituciones vascas están obligadas a elegir

que cargue la responsabilidad sobre los hasta ahora violentos o una convivencia

de culpa los términos medios serán siempre favorables a la justificación retrospectiva de la trayectoria etarra en este caso puntualizo

ninguna guerra sino al respeto escrupuloso de nuestros derechos individuales al respeto escrupuloso de nuestros derechos ciudadanos y a la libertad tal como descarnadamente escribía

preocupados explicaba iñaki unzueta en ese artículo que en el nacionalismo radical no hay un reconocimiento moral de las víctimas y que perseveran en el negacionismo el objetivo es enmascarar escribía

a lo acontecido el nacionalismo rádical escribía persiste

la pluralidad de metas y excluye a una parte de la sociedad no hace mucho pernando barrena utilizó el término suceso para referirse

su catadura moral y que su supuesto rechazo de aquel atentado pero no del resto es profundamente falso e hipócrita no hace mucho

afirmó que eta es consecuencia de un conflicto político que es

como justificar a eta y laura mintegi la semana pasada volvió a hacerlo

fernando buesa fue muerto por causas políticas evitables por no haber habido suficiente diálogo que es como decir que fernando buesa

como explicaba perfectamente este martes pasado josé maría ruiz soroa en un artículo de opinión

sino todos los que no quisieron dialogar con él para solucionar su conflicto

incluida en fin cualquier cosa les vale con tal de no condenar a eta lo cierto es que los representantes políticos de eta aquí sentados siguen sin condenar

siguen sin pedir perdón público los asesinatos fueron públicos y sus justificaciones fueron públicas no lo olvidemos y sin admitir su complicidad

pretenden confundirlo todo y salir impunes quieren lavar su terrible historia de terror y violencia quieren maquillar su pasado

a nosotros a los demócratas nos toca recordarles que están mintiendo lo cual exigirá un esfuerzo militante que rechace admitir sus historias inventadas y los hechos tergiversados hasta lograr que se haga justicia y sean derrotados los criminales y sus ideas criminales

en ningún caso un injusto empate moral que de ningún modo sea lo mismo haber asesinado que haber sido asesinado por tanto

como siempre la hemos dado es un inmenso error que hoy estén en las instituciones los representantes políticos de eta y que estén sin haber condenado y sin haber deslegitimado el asesinato de sus conciudadanos

estado y sociedad debemos oponer la resistencia precisa a cualquier tipo de impunidad

defender la democracia y la dignidad de la sociedad incluidas obviamente las víctimas del terrorismo

comparte los principios rectores para un modelo de fin de eta sin impunidad planteados en su momento por la fundación de víctimas del terrorismo y otras asociaciones al fin y al cabo son los principios que siempre hemos defendido no fueron las negociaciones de argel los pactos de lizarra o las conversaciones de loyola

tampoco los gal o la guerra sucia sino la aplicación estricta de la legalidad vigente incluida

la colaboración internacional la movilización social y las actuaciones policiales y judiciales se trata de perseverar en ello si todo

bien o nos fue bien para debilitar a la banda terrorista por qué cambiarlo defendemos una política penitenciaria aplicada de manera estricta no laxa nuestra opinión es que el gobierno de españa en el desarrollo y aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados

debería condicionar el acceso a planes de reinserción o la obtención de beneficios penitenciarios al cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos por parte del preso desvinculación definitiva y pública

petición de perdón público a las víctimas y a la sociedad por sus actos delictivos asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue

con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos queremos que la colaboración con la justicia sea exigible a los presos que soliciten acercamiento o cambio de grado o cualquier ventaja del régimen penitenciario queremos que la ley penitenciaria se aplique de manera

tienen una dimensión pública porque los asesinados fueron asesinados para imponer un proyecto político antidemocrático y para suplantar a la sociedad por lo que escribir por parte de los presos de eta una petición de perdón privada para acceder a beneficios penitenciarios no puede ser

y condena de la historia de eta es una exigencia y condición democrática

sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación alguna en el juego democrático es decir deben condenar la historia

la tentación de pedir a las víctimas del terrorismo generosidad instándoles a que sacrifiquen sus legítimas reclamaciones y renuncien

esta petición tenemos que decirlo es una forma de chantaje moral voy acercándome

para decir que son los terroristas y los portavoces políticos de los terroristas

nuestras normas asumir nuestras reglas cumplir nuestras leyes y respetar nuestra constitución y nuestro estatuto

son ellos quienes deberán aceptar nuestro estado de derecho lo que precisamente hemos defendido durante años

determinados grupos políticos de esta cámara están enfrascados en la constitución y puesta en marcha de una ponencia que llaman

reiteramos hoy aquí también en este pleno que upyd no participará

el año pasado y como lo hemos dicho siempre por tanto

eh bildu sino también porque no tiene como objetivo derrotar a eta y deslegitimar sus ideas porque no es lo que necesitamos para lograr

y la convivencia cabe recordar que no estamos en guerra y cabe recordar también que la convivencia no es otra cosa que el estado de derecho a la legalidad vigente debemos decir también muy claramente que esta ponencia parlamentaria servirá para que se hable de los asuntos

nosotros ya dijimos que no apoyaríamos ni ponencias ni iniciativas que tuvieran como objetivo fundamental hablar de lo que interesa a batasuna o resolver sus problemas es decir nosotros no vamos a asumir su agenda ni sus

históricas no somos los demócratas quienes debemos acercarnos a las posiciones de los que siguen sin respetar la democracia son ellos los que deben aceptar nuestra legalidad vigente nuestro estado de derecho y nuestra democracia no hay que inventarse por lo tanto nada

y la convivencia no hay que caminar por caminos que discurran fuera de la normalidad democrática no debemos asumir como propia la agenda de la izquierda abertzale y esa ponencia pretende que todos la agenda de batasuna y upyd no va a entrar en ello insisto para ir terminando no hay que inventarse caminos que discurran fuera de la normalidad democrática nuestras obligaciones las obligaciones de los demócratas como representantes políticos son defender la legalidad vigente y el estado de derecho y proponer cada cual las reformas legales que considere defendiendo siempre y exclusivamente la voz

es la del estado de derecho y la democracia la derrota de eta no la hemos logrado aún en esto deberíamos concentrarnos nuestra tarea la tarea de los demócratas más que liarnos en lo que solo a ellos interesa es hacer que eta se disuelva incondicionalmente y para siempre

que pida perdón que reconozca el daño causado y que colabore con la justicia para aclarar los más de trescientos crímenes que siguen sin estar resueltos los partidos políticos democráticos deberíamos concentrarnos y centrarnos en ello en defender un final de eta sin impunidad sin medidas de gracia sin enjuagues antidemocráticos sin chantajes con memoria

en conclusión qué es lo que nos toca a los demócratas aquí presentes defender el estado de derecho y la legalidad vigente defender las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos

la ley de partidos políticos aplicar de manera estricta que no laxa la política penitenciaria incluyendo la exigencia a los presos etarras

a ningún tipo de beneficio penitenciario acercamiento o plan de reinserción debemos los demócratas dar los pasos necesarios

todavía no resueltos a día de hoy esto es

los demócratas defender la democracia

defender en definitiva lo que los demócratas siempre hemos hecho

a los servicios auxiliares de eta es decir

defender la voz y la palabra nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den basagoiti jaunak

la solicitud de este pleno monográfico en los términos planteados por los proponentes es revelador y demuestra

la culpa que tienen los convocantes con una de las etapas más negras de toda la historia del país vasco su supuesto conflicto que esta mañana han vuelto aquí a justificar les ha servido para apuntar para justificar

sí sí tienen ustedes culpa tienen mucha culpa en los crímenes

porque por encima de las leyes por encima de la democracia incluso por encima de la vida de las personas intentan y han intentado imponer su independencia y su

y si no se traga con sus objetivos dicen que hay un conflicto que justifica el terror por eso hoy esta mañana

a las personas a las que les han robado la vida de manera absolutamente injusta e injustificable con la excusa

con la idea verdadera de imponer sus tesis y si no conflicto me voy a referir a lo importante a las víctimas

es lo importante porque aquí nadie justifica al gal ni la tortura ni nada parecido y en dos mil trece ustedes

real que tenemos y por eso les voy a decir que escuchen a todos a toda la cámara porque creo que lo que voy a hacer ahora nunca se ha hecho en este parlamento en su historia se ha hecho en este parlamento y atiendan

con respeto los que mandan en bildu porque tienen pecado tienen pecado con estas personas con sus familias y con el conjunto de la sociedad jean serge diego salvá

eduardo puelles ignacio uría luis conde

fernando trapero raúl centeno carlos alonso

bonifacio martín julián embid joseba

antonio molina juan carlos beiro silvia martínez

juan priede javier mijangos ana arostegui

ramón díaz juan manuel gervilla francisco cano

luis portero josé luis ruiz manuel indiano josé ángel de jesús

francisco casanova josé maria corta juan maría jáuregui

jesús pedrosa josé luis lópez de la calle jorge díez fernando buesa pedro antonio blanco manuel zamarreño alfonso parada tomás caballero

josé luis caso josé maría aguirre daniel villar

josé maría garcía luis amperio francisco javier gómez modesto rico

modesto rico domingo puente rafael martínez

ramón doral francisco tomás y valiente fernando múgica luciano cortizo josefina corresa martín rosa félix ramos florentino lópez del castillo

santiago esteban manuel carrasco jesús rebollo enrique nieto eduardo lópez

alfonso morcillo josé santana francisco veguillas

cesar garcía josé manuel olarte juan josé hernández miguel peralta

juan romero pedro robles domingo olivo fidel dávila

manuel calvo javier baro ángel gonzález emilio castillo josé ramón domínguez josé antonio santamaría miguel miranda

ricardo gonzález antonio heredero juan manuel martínez josé manuel fernández

juan josé carrasco antonio martos enrique martínez

julia ríos antonio ricondo eutimio gómez

antonio ricote juan antonio núñez ramón navia francisco carrillo juan antonio querol virgilio mas manuel broseta josé

pedro carbonero el niño fabio moreno juan carlos trujillo eduardo sobrino

francisco cebrian alfonso menchaca francisco gil carlos pérez

pedro domínguez luis claraco jesús sánchez manuel pérez

juan chincoa francisco álvarez francisco robles maría villamudria josé manuel cruz manuel etxebarria luis aragó

luis garcía luis achurra vicente lópez francisco pérez miguel marcos eduardo hidalgo juan gómez juan josé escudero

carlos arberas luis sánchez josé manuel alba

josé lasanta rafael san sebastián francisco

juan pedro gonzález carmen tagle luis reina

luis hortelano josé montes juan antonio garcía

josé calvo engracia gonzález josé antonio barrado josé aldolea luis delgado bilbao cristóbal díaz juan josé pacheco julio gangoso

pedro ponte josé antonio ferri antonio fernández

antonio gómez francisco espina luis azkarraga pedro ballesteros

silvia ballarín josé ignacio ballarín pedro alcázar antonio mateo maria cruz

manuel ávila cristóbal martín rafael mucientes antonio ligero antonio lópez pedro galnares silvia vicente jordi vicente xavier josé valero bárbara serret luis salto luisa ramírez consuelo mercedes moreno rafael morales matilde martínez

daza felipe caparrós susana cabrerizo sonia cabrerizo rosa balldellou milagros amez carmen pascual

félix peña juan fructuoso antonio gonzález

sánchez manuel rivera josé ángel ramos josé antonio peña francisco rollo

antonio lancharro santiago iglesias ángel de la higuera jesús

josé calvo juan ignacio calvo carmen bella francisco muriel carlos marrero

francisco casillas antonio ramos manuel fuentes enrique moreno juan mateos

josé antonio álvarez manuel trigo cristóbal colón

fernando amor agustín ruiz fausto escrigas antonio trujillo juan merino

ignacio montes eugenio recio vicente romero josé millarengo juan garcía esteban del amo francisco miguel

alfredo aguirre moisés herrero francisco rivas

francisco javier fernández juan enríquez luis asensio

josé luis veiga agustín pascual victoriano collado

diego torrente luis hoyo juan flores ángel rodríguez antonio velasco

eduardo navarro pablo garraza francisco javier collado

antonio de vicente ángel martínez manuel carrasco

manuel garcía jesús blanco juan maldonado eduardo vadillo julio segarra maría dolores ledo pedro barquero aniano sutil joaquína llanillo aníbal izquierdo

francisco gonzález domingo garcía cesar uceda

hernández continuo

juan seronero jesús ordóñez alfonso lópez antonio cedillo

rafael vega daniel enríquez luis manuel allende

pablo fernández vicente garcera ramiro carasa alfonso

benigno garcía manuel hernández santiago gonzález

josé olaya guillermo tevar manuel rodríguez antonio noguera oswaldo rodríguez francisco francés vicente sánchez juan costas

ramón romero josé luis de raimundo josé maría ryan

vicente zorita miguel zunzunegui sotero mazo josé

juan de dios doval juan manuel garcía felipe extremiana jaime arrese lorenzo motos carlos garcía josé luis vázquez ángel prado

josé antonio merenciano jesús hernando sergio canales benito morales

ramón coto alfonso martínez miguel hernández mariano gonzález antonio garcía

francisco lópez ramón ledó aurelio navio antonio gómez joaquín becerra

ángel postigo tomas sulibarria francisco ruiz

dionisio villandangos josé manuel rodríguez

ramón baglieto josé antonio moreno josé espinosa

ángel astuy victorino villamor josé martínez antonio

luis domínguez alfredo ramos josé miguel palacios francisco

antonio ales fernando espinola manuel fuentes antonio mesa

pedro goiri luis maría uriarte sixto holgado

antonio lópez manuel ferreira antonio nieves

antonio pastor emilio lópez moisés cordero jesús maría colomo

diego alfaro héctor muñoz ángel baños andrés valera

gómez jesús abalos antonio pérez antonio peña josé miguel maestre

juan bautista peralta miguel orenés adolfo mariñas

miguel chávarri benito arroyo sergio borrajo josé antonio vivo josé díez félix de diego josé fernando

antonio ramírez hortensio gonzález ciriaco sanz

josé maría herrera francisco berlanga josé luis vicente lisardo sanpíl josé maría arrizabalaga pedro garrido

manuel león alejandro hernández eliodoro arriaga

mariano criado rafael recaola josé luis legasa

epifanio benito andrés silverio luciano mata

francisco de asís liesa ramiro quintero josé zafra

josé antonio ferreiro aurelio salgueiro alfonso estevas josé garcía juan manuel sánchez ramos juan antonio pérez javier jauregui

francisco martín antonio garcía martín merquelán manuel lópez juan antonio marcos

esteban beldarrain josé maría panizo josé del val miguel raya joaquín ramos manuel

josé díaz augusto unceta ángel rivera antonio

javier ybarra manuel orcera antonio galán constantino gómez luis sanz antonio palomo

luis carlos albo antonio frutos miguel gordo

antonio echevarria manuel lópez germán aguirre jesús pascual

mariano román domingo sánchez fernando llorente andrés segovia josé ramón morán

luis santos argimiro garcía jerónimo vera

y josé pardines esto lo tenían que escuchar ustedes no hay ni una sola excusa para haber asesinado a todos estos hombres

no hay ninguna justificación para tanto crimen con nombre y con apellido y con autoría de eta y más del noventa por ciento han sido cometidos en democracia cuando los vascos decidían libremente su futuro mintegi andrea

jauna defender que los asesinatos eran evitables y son consecuencia de un conflicto es indecente y es totalitario siguen

esta mañana han sido incapaces de condenar a eta y siguen justificando lo que ha hecho eta siguen justificando

que todas estas personas estén asesinadas no hay ni un solo acto de contrición

y hablan de soluciones y le digo que su postura del conflicto de justificar los atentados es indecente y totalitaria aunque lo hagan con una voz más suave o intentando ocultar hoy

esa actuación es indecente porque da sentido a los atentados

porque si no consiguen imponer sus tesis la amenaza y la justificación de la amenaza por eso les digo que a ustedes dirigentes de bildu que están aquí salgan salgan ahí fuera y empiecen a pagar lo mucho que le deben a esta democracia y a esta sociedad

bien fácil salgan ahora a la puerta de este parlamento y reconozcan que no hay ninguna razón que justifique matar a una persona dígalo públicamente alto y claro y lo importante no es que digan que hay sufrimiento

lo importante es que reconozcan su culpa y que digan que todo fue

de una vez por todas a eta lo auténtico lo realmente auténtico

lo auténtico es que digan que no se puede pegar tiros a una persona que piensa diferente lo auténtico es que digan que no es justificable asesinar a nadie por pensar distinto dígales salgan ahí fuera y dígales a esta sociedad

y sus aplausos de los atentados dígale a esta sociedad que ustedes razón que se equivocaron que lo que hicieron estuvo rematadamente mal y que esos comportamientos indecentes como el suyo no tienen

no vengan a este parlamento a blanquearse y a quitarse de encima una responsabilidad que les corresponde que les corresponde de principio a fin vayan

a sus maridos a sus mujeres y a sus hijos que fueron asesinados por culpa de un supuesto conflicto que ellos podían haber evitado dialogando

ante ellas y dígales que les quitaron la vida por culpa de su particular conflicto y diálogo

personas inocentes todas que fueron asesinadas de un tiro en la nuca en la puerta de su casa

con sus hijos en plena calle o en el bar de la esquina con un coche bomba o con un tiro en la nuca personas que hacían una vida absolutamente normal tienen ustedes la caradura de decir que estas personas son víctimas del conflicto

ochocientos cincuenta y siete personas fueron asesinadas por una banda terrorista que ha contado siempre con su amparo y con su apoyo para construir su dictadura independentista vasca y hoy siguen sin rechazar

sin condenar miren se puede discrepar se puede discrepar y se puede discutir de lo que se quiera

no se puede secuestrar no se puede asesinar y ustedes

que ha hecho todo esto durante cuarenta años y ustedes siguen sin ser capaces

dejen de faltar el respeto a esta sociedad y empiecen reconociendo el pecado

señora presidenta lehendakari componentes del gobierno señorías el grupo parlamentario de eh bildu

un debate sobre lo que ellos denominan el conflicto político vasco pero leyendo el enunciado de su propuesta

se comprueba con claridad que lo que pretenden es justificar la siniestra

y a la vez justificar el apoyo que su mundo el mundo de batasuna dio

a la banda terrorista eta y a la vez intentar también blanquear

ustedes quieren un pleno monográfico de exculpación han pasado de defender

a defender ahora la socialización de la responsabilidad

que tiene responsabilidades concretas y los socialistas no vamos a colaborar en esta operación de desmemoria vamos a defender siempre principios de verdad memoria y justicia y no vamos a permitir que ustedes pretendan equiparar responsabilidades y sacudirse las responsabilidades de su pasado porque

ustedes no van a conseguir rescribir la historia la verdad

la van a escribir los demócratas las instituciones democráticas la ciudadanía vasca la ciudadanía vasca que luchó por la libertad por la convivencia

la van a escribir las víctimas que no se doblegaron ante la dictadura del terror

y la verdad es que en euskadi había gente que asesinaba

asesinada la verdad es que en euskadi no hay presos políticos

y por cometer asesinatos y actos terroristas y la verdad es que en euskadi había gente que defendíamos la democracia la libertad

y otros que querían imponer su proyecto totalitario a través de la violencia y del terror al conjunto de la sociedad vasca la verdad es que en euskadi

el autogobierno las reglas de juego que nos hemos dado los vascos y las vascas y otros

e imponer su proyecto totalitario a través del terrorismo hasta hace poco

que gritaba eta mátalos y otros que sufríamos que sufrían las consecuencias de esta amenaza hasta hace poco había gente de sus filas que decían como el militante de ekin ugaitz

que los concejales del pp y del partido socialista

el etarra jose luis barrios juzgado por haber intentado volar la casa cuartel de granada de la guardia civil que decía en público

y mujeres de los guardias civiles lo eran porque no eran civiles ni inocentes

todas estas cosas que pasaban en euskadi ante el asesinato la extorsión el chantaje ante todas estas barbaridades que se decían ustedes callaban cuando no consentían o cuando no jaleaban lo que pasaba por eso hoy

usted y su grupo tienen una buena oportunidad en este parlamento para rectificar para decir algo tan sencillo como esto nos equivocamos reconocemos nuestro error

porque señorías recientemente su compañera de bancada la señora

dijo que todos hemos sido parte del problema y todos

y nosotros aceptamos que todos tenemos que ser parte de la solución pero negamos radicalmente

no tuvimos la misma responsabilidad porque entre otras muchas cosas que podría decirle los asesinados los extorsionados los amenazados no eligieron ser víctimas

los que decidieron apoyar y justificar el terrorismo lo hicieron plenamente conscientes y fue una decisión personal de cada uno de ellos

y en euskadi tenemos muchos problemas y los hemos tenido en el pasado pero el principal problema

euskadi ha sido una banda terrorista que ha sembrado la historia de actos terroristas de asesinatos de extorsión

y señores de eh bildu tienen derecho a evolucionar y nosotros nos alegramos y le animamos a que lo hagan pero tienen que seguir dando pasos

y no pueden exigirnos a los demás que flexibilicemos nuestras exigencias éticas y democráticas

son ustedes los que tienen que cambiar los que tienen deberes pendientes por cierto

que fernando buesa y otras muchas víctimas no murieron por una rara enfermedad política no

les asesinaron por defender la democracia

la convivencia por oponerse a los postulados totalitarios de eta

con la justificación de que había un supuesto conflicto político no resuelto en euskadi como en todas las sociedades democráticas hay muchos conflictos

pero salvo algunos ha nadie se le ha ocurrido y espero que a nadie se le ocurra en el futuro tomar las armas para defender

las actividades terroristas nunca tienen justificación y cuanto antes lo admitan ustedes mejor

para defender sus posiciones porque no hay razones nunca para matar al que piensa diferente hace muchos años ya quedó escrito que el que mata a un hombre

quieren convertir la derrota de eta en un triunfo político de quienes

justificación y cobertura y no lo van a conseguir porque no vamos a dejar que lo consiga

y no pagó precio político a eta mucho menos ahora va a pagar precio a ustedes

justificar su pasado con el argumento de que la sociedad vasca hemos padecido y padecemos la imposición de españa

el marco jurídico que nos hemos dado que regula nuestras libertades nuestra convivencia nuestro autogobierno lo hemos

libremente los vascos y las vascas en todo caso si hay algún conflicto por resolver será un problema

porque no ha habido un intento de imposición de españa la verdad es que fue eta

la que quiso imponernos los designios a la sociedad vasca la que quiso imponernos un proyecto totalitario la verdad

la que quiso acabar con el pluralismo vasco la verdad es que fue eta y no la democracia española la que quiso acabar con las instituciones de autogobierno fue eta y no el estado de derecho y la democracia la que atentó de forma intolerable

de miles de personas ha sido eta y no el estado de derecho y la democracia

reventó con bombas la voluntad intentó reventar con bombas la voluntad de los ciudadanos expresadas en las urnas

es cuando hemos podido empezar a abrir un nuevo tiempo en nuestra sociedad

que nadie ha tenido que dejar de ser nacionalista ni independentista ni autonomista

o de derechas para defender sus proyectos y también para poder hablar de una convivencia plena

hemos conseguido acabar definitivamente con las actividades terroristas pero esto es lo que ha cambiado en euskadi porque lo demás sigue siendo algo que habíamos conquistado cuando conquistamos definitivamente la democracia

de tranquilidad que es verdad que tenemos que aprovechar primero para un objetivo fundamental hacer irreversible el final del terrorismo y acabar definitivamente con eta pero también para construir el futuro juntos y consolidar la paz

y la convivencia tenemos que hacerlo sin pagar peajes sin caer en síndrome de estocolmo porque a eta no le debemos nada

reitero e insisto que ustedes tienen derecho a cambiar

del mismo modo que los miembros de eta que

a muchas familias y a muchos ciudadanos en euskadi tienen derecho a reinsertarse y a alejarse de la violencia cuando cumplan sus penas reconociendo el daño causado

lo mismo que ustedes se han acogido a la legalidad para hacer política es muy curioso que quien se haya acogido a la legalidad

la posibilidad de acogerse a la legalidad para recorrer el camino

ustedes tienen derecho a cambiar pero tienen deberes pendientes tienen que reconocer que fue una equivocación su apoyo y su justificación de la violencia y ustedes y especialmente aquellos que asesinaron y cometieron actos terroristas tienen que reconocer

en euskadi la historia no comienza con ustedes y con su incorporación ahora a las instituciones no comienza con su decisión de afectar la legalidad y las reglas de juego democráticas que nos hemos dado auque nos parece importante que lo haga tendrán que reconocer que ustedes llegaron tarde a la democracia y que también llegaron tarde a la defensa de los derechos humanos espero que

para recuperar el tiempo perdido por lo tanto bienvenidos al juego democrático

bienvenidos al respeto a las reglas de juego y a la legalidad que tanto combatieron y negaron en el pasado bienvenidos a la defensa de los derechos humanos

si dijeran alto y claro que repudian que rechazan las actividades terroristas de eta que repudian que rechazan el asesinato la extorsión el chantaje

también tuvieran la valentía de pedirle a eta que desaparezca definitivamente

hemos conseguido acabar con las actividades terroristas fruto de la política y firmeza democrática y tolerancia cero que hemos practicado y defendido

la acción policial la colaboración internacional la resistencia cívica el ejemplo de la ciudadanía y de las víctimas la presión de la sociedad vasca la que ha conseguido acabar con todas las actividades terroristas

y ustedes tienen que ser capaces de reconocer los errores de su pasado le decía que todo no empieza con ustedes en las instituciones nuevamente este parlamento

en el combate a eta para conseguir acabar definitivamente con las actividades terroristas pero también lleva mucho tiempo trabajando en políticas de memoria

asentar la convivencia que es el reto fundamental que tenemos ahora

dando respuesta a las reivindicaciones de las víctimas de eta también a las víctimas de otras organizaciones terroristas desaparecidas el gal el batallón vasco español

porque fueron incluidas en la ley de víctimas del terrorismo pero también este parlamento con el gobierno socialista

empezó a trabajar y concreto propuestas para atender y dar respuesta a las reivindicaciones de otras víctimas

lo fueron como consecuencia de algunas actuaciones o errores de funcionarios públicos estamos trabajando para que podamos

desde una política de memoria verdad y justicia sin equiparaciones pero trabajando con un objetivo fundamental que es poder mirar al futuro juntos para construir el futuro entre todos

nosotros no solamente hemos parecido los zarpazos del terrorismo hemos tenido

hemos tenido que acompañar a muchos compañeros que fueron atacados que fueron coaccionados pero también hemos arriesgado mucho para conseguir acabar definitivamente con las actividades terroristas

a mirar al futuro estamos dispuestos a trabajar todos juntos

y la convivencia pero lo haremos reivindicando y defendiendo siempre sólidos valores éticos y democráticos

ético de pluralidad democracia

reivindicando las reglas de juego que nos hemos dado porque si algo

que regulan la convivencia y la actividad política y la actividad ciudadana siempre buscaremos el máximo dialogo y el máximo consenso

que nuestra posición de exigencia a su grupo no alberga la menor intención de alimentar confrontaciones

posiciones éticas y democráticas claras porque si no nos equivocaremos en lo que tenemos que hacer para el futuro porque sino estaremos construyendo

no vamos a colaborar en esa tarea nosotros queremos que ustedes participen en un proceso que tenemos que abrir juntos para construir el futuro pero sobre posiciones claras no sobre actitudes confusas sobre valores éticos y democráticos profundos de tolerancia

tenemos todavía un reto pendiente un objetivo fundamental como sociedad que es conseguir que eta desaparezca definitivamente y les vuelvo a emplazar reclámenle sin subterfugios

a eta que desaparezca hoy tienen en este pleno una buena oportunidad de hacerlo nosotros queremos que este pleno sea un pleno en el que pongamos las bases sobre las que podemos trabajar para el futuro

ético y democrático sobre el que podemos trabajar juntos por eso pensamos que cada uno tiene que retratarse con claridad

nos parece que hoy no es el día de discutir diferencias o posiciones sobre política penitenciaria

considerar que tienen que discutirse en este parlamento

lo importante de este pleno reiteramos es poner las bases sólidas y firmes para que podamos juntos trabajar en consolidar definitivamente la desaparición de eta

y la convivencia por eso los socialistas vascos vamos a proponer una única resolución

esta tarde una única resolución que además esperamos

con otros grupos parlamentarios para fijar ese suelo firme ético y democrático imprescindible que regule y dé garantías de éxito al trabajo que tenemos que hacer en esta cámara a ese trabajo que nos proponemos desarrollar

exigencia a eta de que desaparezca definitivamente sin ninguna contraprestación respeto a las reglas de juego democráticas incluso para proponer y defender el cambio de las mismas memoria verdad y justicia a todas las víctimas defensa de valores

y acuerdo para la concordia ciudadana basada en la pluralidad en la tolerancia

estos son nuestros principios son los que hemos defendido siempre

luego se votarán las resoluciones y espero que ustedes los parlamentarios de eh bildu estén a la altura de las circunstancias y apoyen con sus votos la resolución que vamos a proponer nosotros queremos construir el futuro de euskadi juntos

pero no al precio del olvido no al precio de renunciar a la defensa de valores éticos y democráticos no al precio como ha ocurrido con algunos partidos integrados en su coalición de rebajar nuestras exigencias y nuestros posicionamientos nosotros

pero no vamos a aceptar que se rescriba la historia no vamos a aceptar que se trastoque la verdad no vamos a pagar el precio de que ustedes

los socialistas vascos no vamos a colaborar con ustedes en nada de esto vamos a ser exigentes y acabo

señores parlamentarios y parlamentarias de eh bildu especialmente los que

a lo que se llamaba la izquierda radical

para que no pierdan el tren del futuro tienen una oportunidad para que en este parlamento

asuman las responsabilidades de su pasado y se comprometan con todos los demás a construir el futuro sobre un suelo ético y democrático que todos deberíamos compartir

es que es lo que puedo y debo deducir si no hay una reflexión una consideración ética política y democrática sobre

concreta referida a las más de ochocientos personas asesinadas

una reflexión ética política y democrática

es consecuencia de un fracaso qué puedo o qué podemos deducir si no se hace esa reflexión

pues que la apuesta inequívoca por vías políticas y democráticas

es consecuencia del fracaso de la violencia que lo demás no se hubiera hecho nik

cuando constituimos la ponencia que en esta legislatura todavía no hemos

esa constitución espero que sea en breve

clara la misión de esa ponencia y lo que no tenía que abordar esa ponencia la ponencia debe abordar principalmente

por supuesto la defensa de los mismos por supuesto determinarla responsabilidad de lo que han podido ser las vulneraciones

de futuro sentar las bases y principios de memoria y de no repetición qué es lo que no debe abordar

verificar la autenticidad de la decisión de la organización eta de octubre de ya hace

en la que anuncia el cese definitivo no es nuestra misión y a la vez décimos no es misión ni objetivo de esta ponencia abordar un debate sobre el marco jurídico político o los derechos colectivos que le puedan asistir al pueblo vasco

y diseñaremos otras zonas de trabajo otras formas de trabajar esa es la misión yo sí estoy de acuerdo con quienes piensan

si en el día de hoy cuando menos sobre esas bases éticas políticas y democráticas pudiéramos tener un punto de encuentro sería un gran avance un gran avance en la perspectiva de que estamos

algunas pueden optar libremente por participar o no participar en ella o alguna formación pero sí hay un ámbito de trabajo un ámbito en el que lo primero que hay que tejer es confianza desde el respeto para poder conocer también las posiciones de quien

muy lejano quizás o no tan lejano y sentar esas bases nik uste dut hori dela gure egitekoa

es literalmente definir una hoja de ruta integral con relación a la raíz del conflicto y sus consecuencias

se den las condiciones propicias para alcanzar un gran acuerdo de estas características sin embargo deberíamos aprovechar esta ocasión

la pregunta es hacia dónde podemos dar ese paso cómo podemos avanzar en mi opinión

podemos y debemos intentar avanzar en una dirección probablemente en la única posible generar confianza hoy

nuestras relaciones políticas es la desconfianza una desconfianza que tiene su origen en los efectos destructivos que han provocado décadas de violencia y crispación el consenso es la principal vía para avanzar en materia de convivencia

la desconfianza es el obstáculo previo que impide cualquier avance metodológicamente y como primer paso

debemos crear un clima de confianza entre todas las tradiciones políticas de este país al menos para esta materia de la convivencia

grandeza política y visión de futuro habremos de dejar al margen quien las tuviere tentaciones cortoplacistas

o ventajas inmediatas pensemos en nuestras generaciones presentes pensemos en las generaciones venideras pensemos en las víctimas

a las que se les han vulnerado sus derechos como ser humano hasta arrebatárselos incluso pensemos en lo que puede ser este país sin la rémora

seguro que esos nobles deseos nos dan lucidez determinación y fuerza para estar donde debemos estar vivimos una oportunidad histórica por la que han luchado muchos vascos y vascas el final de la violencia

libre de amenazas que nos ayude a que sea una euskadi de personas libres una euskadi en la que todas las expresiones políticas

conviene que comencemos reconociendo lo positivo de nuestra situación

y la coacción permítanme que les recuerde esta evidencia lo hago porque no es bueno que la dificultad de las tareas que nos aguardan

que ha luchado que se ha librado del odio que ha cumplido con generosidad una responsabilidad que ha llevado a reforzar unos valores individuales y colectivos

estas personas merecen nuestro reconocimiento se merecen que afrontemos el futuro con una mirada esperanzada es mucho lo que nos une quiero pensar que aunque no sea más que íntimamente hemos recorrido mayoritariamente juntos un camina de madurez como sociedad ahora

de la pacificación nos plantea estoy plenamente convencido de ello estoy convencido de que vamos a ser capaces de superar la desconfianza

y generar la confianza que necesitamos que la convivencia nos demanda mesfidantzek politika neutralizatu egiten dute

los miedos y las desconfianzas son identificables en la mayoría de los casos justificadas estas desconfianzas

solo se me ocurre una manera de superar este problema tenemos que hablar tenemos que conversar entre nosotros y nosotras tenemos que hacerlo con claridad propongo que hablemos claro propongo el tratamiento de la claridad propongo responder con claridad a las cuestiones que son

por parte de nuestros antagonistas políticos por eso quiero comenzar con una precisión sobre la naturaleza del conflicto vasco hablaré claro lo considero importante siempre he mantenido que el conflicto vasco

en relación con nuestra identidad y autogobierno es algo diferente del en su caso si cabe llamarlo conflicto por quien así lo quiera llamar

no es la consecuencia natural de un conflicto político sino su perversión

es la expresión más terrible de la intolerancia ahora bien también sostengo con la misma convicción que la desaparición de la violencia de eta

no podemos permitir que eta imponga su interpretación del conflicto vasco como tampoco debemos concederle el dudoso privilegio de que sea quien decida cuándo y cómo han de abordarse asuntos para los que debemos encontrar una solución

como anuncié en el discurso de investidura a lo largo de la presente legislatura iniciaremos

sobre el futuro de nuestro autogobierno digo esto con la intención de clarificar los términos de este debate no para mezclarlo con la cuestión de la pacificación

como se ha podido comprobar durante todos estos años el cese definitivo de la actividad violenta de eta era una condición indispensable para poder empezar a abordar con seriedad y en profundidad la convivencia libre y democrática en el seno de la sociedad vasca estoy también convencido

nos ayudaría a eliminar obstáculos nos ayudaría a allanar el camino del dialogo entre las fuerzas políticas vascas de cara a la consecución de un acuerdo de base sobre el futuro político de nuestro pueblo berriro diot

propongo que nos comprometamos a hablar claro propongo que de forma clara incluso solemne uno y otros nos escuchemos expresar palabra

nos comprometemos a que el fin de la violencia de eta no suponga pasar página sin clarificación reconocimiento ni critica explicita sobre lo sucedido

no queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado nos comprometemos a no re escribir

o las vulneraciones de derechos humanos así como a oponernos a ella y rechazar su uso nos comprometemos a que sin equiparaciones todas las víctimas también las producidas por los abusos policiales reciban el reconocimiento y la reparación que merecen

nos comprometemos a que el fin de la violencia se trasforme en integración y vertebración social de la convivencia

dentro del marco de posibilidades legales la normalización social aborde la cuestión de los presos y la política penitenciaria

nos comprometemos a que el fin de la violencia suponga la paz y una normalización social de la convivencia

en cuál de estas formulaciones debe poner especialmente el acento y el subrayado de forma que contribuya a incrementar la confianza porque se trata de unir

las políticas públicas de la memoria no pueden llevarse a cabo como si los poderes públicos quisieran fijar definitivamente el sentido de los acontecimientos

en una democracia la escritura de la historia solo puede hacerse en un marco de pluralismo bajo la mirada vigilante y crítica de diversas

no corresponde al legislador no corresponde a nosotros y nosotras señorías fijar de manera autoritaria una regla para la interpretación del pasado

el deber de la memoria ha de acompañarse de una aceptación de la complejidad histórica no es lo mismo la verdad judicial que la verdad política o la verdad de los historiadores no siempre coinciden exactamente ni tienen porqué coincidir

printzipio etikoak partekatzen ditugula aitortuz segundo el espacio natural para hacer este ejercicio es

les invito a constituirla y a trabajar sobre este terreno como ejercicio de acercamiento de posturas

lo que necesitamos que digan los otros para que se pueda ampliar el ámbito de la confianza digámonoslo abiertamente hablemos claro

al riesgo constante de la división y la crispación política mediática y social no es bueno para nadie

de un modo discreto y leal cuarto en este proceso todos debemos decir cosas significativas que implícita o explícitamente puedan conllevar incluso algún tipo de autocrítica la que a cada uno corresponda si así fuera y desde luego

en la manera en la que hayamos gestionado todo este tiempo no autocrítica desde luego en la asunción de ninguna culpa

o justificación y no desde luego en esa asunción de culpa en la simple y llana conculcación de los derechos humanos y del derecho fundamental quiero ofrecer la disposición de mi gobierno

eskerrik asko legebiltzarburu andrea hemos realizado un discurso desde nuestra más profunda convicción no hemos justificado nada no hemos legitimado nada simplemente hemos hecho genuina y pormenorizada constatación

desde nuestra perspectiva desde el mandato que nos dio la sociedad la ciudadanía para que defendamos aquí dónde he justificado qué tal vez

ya vale nahikoa da una lectura una evaluación un diagnóstico impecable desde el punto de vista democrático desde el punto de vista

y del respeto además que merecen otros puntos de vista no hay conflicto político es ciertamente difícil que ustedes y nosotros

hablan de una pugna de relatos no se puede rescribir la historia considero que en la posición que ustedes se encuentran

se están negando a ustedes mismos la posibilidad de realizar un relato están rechazando la mera posibilidad de explicar lo que ha sucedido aquí ningún observador futuro desapasionado que se acerque a la realidad que se acerque a la historia de este país va a entender algo

retirada cualquier referencia a un contexto a unas causas a unas condiciones a unas consecuencias

políticas introduciremos matices introduciremos puntualizaciones pero la lectura para ser veraz deberá de ser asimismo política de la misma manera que la resolución para que sea práctica deberá de ser política esaten da egindako mina

hace dos semanas conmemorábamos los crímenes del tres de marzo la semana que viene

quiero traer el caso también de un miembro de este parlamento sobre el cual en estos días estamos conociendo nuevos datos es el caso

en referencia a él se está reabriendo su juicio con nuevos datos que implican al presunto autor de los disparos además de a los cargos

que promovieron la acción no podemos recordar a santi brouard desprovisto de su vertiente política de la causa que defendió

le asesinaron estamos justificando con ello estamos justificando con ello algo

económico o la acción de un desequilibrado el móvil fue político así como era político el efecto dramático que se pretendía conseguir

acaso por hacer una reflexión en claves políticas piensan que minimizamos en algún momento lo que sucedió

pero sepan que nosotros no podemos deslindar no podemos desproveer de significado político

señores del pp y del psoe es que ustedes no quieren evolucionar el problema es que no quieren ver la verdad no quieren que se hable sobre la verdad del conflicto

para poder mantener intocable la raíz de este conflicto que no es otra que la negación de euskal herria no ha habido imposición nos decía

precisamente de un marco no tenía alternativa de un marco había posibilidad de habernos dotado de algún otro había otros proyectos políticos

pero no alternativas se nos da lecciones de democracia

no sé si tendremos que conseguir el carné de demócrata en sansomendi en intxaurrondo en la salve

en indautxu nosotros no les negamos

a nosotros nos han elegido para iniciar una cultura del diálogo y una cultura de la resolución sin embargo las posiciones que aquí ustedes defienden señores del pse y del pp

quieren que sean defendidas sus votantes la actitud de máquina del tiempo que ustedes sostienen

no se corresponde con lo que su masa social piensa y desea su posición no atiende siquiera a la realidad social de sus propias filas

que quieren salir de ese pasado que quieren que se evolucione que se den pasos que ustedes se empeñan en obstaculizar ustedes

defienden una posición teledirigida desde madrid desde allí les indican como actuar

miento señor ares hay actitudes en su partido que apuestan por avanzar apóyese en ellas

que estamos en la estadística que simplemente vemos el problema desde fuera que no hacemos una valoración

la consejera de seguridad estefanía beltrán de heredia nos dijo en su primera comparecencia nos trajo el caso de quince ertzainas víctimas mortales de eta

no acabamos de venir de las naciones unidas a ver lo que sucede aquí pero sabemos

de los gobiernos y que uno debe de asumir las responsabilidades y las obligaciones en materia de derechos humanos que le dejan sus antecesores se puede hablar de estrategias en plural político militares incluso

se puede hablar de otras consecuencias directas de una estrategia de sufrimiento como es la política de dispersión de presos vascos política que ustedes

diciendo que cuando lo hicieron lo hicieron por buenas intenciones

de instituciones penitenciarias dieciséis familiares fallecidos